barrio jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko muchas gracias señora presidenta buenas tardes señorías
lehendakari bien pensamos que esta es una iniciativa que ha quedado pendiente se frustró en comisión

interpelación que este parlamentario realizó el pasado pleno de control a la señora consejera de educación y cultura pensamos que hay una posibilidad de que el gobierno diga cosas en materia de deporte diga cosas en materia de su organización de su financiación de su fomento y que lo haga en un plazo breve creo que la disposición

lo comprobamos en la interpelación es buena para ello pero en época de importantes recortes en materia deportiva es necesario actuar estratégicamente para mejorar algo que es básico en una sociedad moderna y una sociedad que debe de ser sana también el deporte

y formas de expresión deportiva y a la vez el trabajo institucional en su fomento y entendemos que este año que dos mil catorce debe ser un año de trabajo

a este parlamento hemos firmado con el grupo mixto upyd una enmienda de transacción que quiere decir lo siguiente

en todos sus niveles y en todas sus categorías desde el deporte base escolar universitario de élite debe ser fomentada y apoyada desde los poderes públicos como una prioridad que forma parte de la vida sana y la convivencia que exige una sociedad moderna y avanzada

todos lo secundamos y apoyamos y a renglón seguido

trabajo al parlamento trabajo que entendemos

insta al gobierno vasco a que en coordinación con las instituciones competentes en materia deportiva realice un informe en el que defina desarrolle un modelo de organización financiación y fomento del deporte que haga viable sostenible cohesionada

compleja amplia llena de clubes asociaciones federaciones

pero que tiene que ser sostenible que se tiene que mantener en el tiempo y que tenemos que preservar ese mantenimiento

enmienda de transacción que el parlamento vasco inste al departamento de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco el competente en la materia a que presente en el presente año envíe a esta cámara ese informe sobre organización financiación y fomento del deporte que sirva de referencia para la mejora progresiva de un modelo estable

efectivamente esos son deberes para el gobierno

esa organización ese entramado complejo el fomento y fundamentalmente la financiación que es de lo que

en la sesión de la comisión de cultura euskera juventud y deportes que celebramos el pasado dieciséis de diciembre y en la sustanciación de la proposición no de ley

de financiación del deporte fueron rechazadas las enmiendas de transacción

de ellas podíamos ver además que las dos propuestas iban en el mismo sentido y el hecho

y por eso nosotros estamos aquí y por eso hicimos el planteamiento a la consejera que el gobierno no realice algo que es una necesidad pendiente en relación con la financiación del deporte ese documento estratégico ese documento de análisis de propuestas que entendemos debe de realizar y que vimos

estaba dispuesto a realizarlo o sea que en ese sentido pues yo creo que

federaciones deportivas provinciales federaciones vascas unión de federaciones clubes fundaciones del deporte conforman deportistas

colectivo que requiere una importante reflexión estratégica en relación con el aprovechamiento de los recursos públicos y la eficacia del gasto público

en la interpelación también los recursos y también la financiación privada bueno eso fue el objeto de la interpelación en aquel momento y también lo que fundamenta la enmienda de transacción que hemos presentado a este pleno

su artículo cuatro instituciones comunes en lo que se refiere a la organización administrativa del deporte dice

que corresponde a las instituciones comunes de la comunidad autónoma vasca el ejercicio de la competencia y aprobar las federaciones deportivas así como su asistencia financiación e intervención y control para garantizar el cumplimiento de sus funciones públicas las funciones públicas que tienen encomendadas esas instituciones que son las federaciones sin menoscabo de su actividad y el artículo tres

en los principios rectores que los poderes públicos garantizarán la práctica deportiva adopción de medidas que incentiven el patrocinio privado del deporte como complemento a la actuación

y que entendemos que puede ser a través de ese trabajo del gobierno

en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma de euskadi para dos mil catorce en la memoria en relación con el departamento

dice algo claro en relación con los ejes de actuación y uno de esos ejes será la estructura asociativa deportiva

ajustando su estructura y funcionamiento a criterios de máxima eficiencia redefiniendo su papel en la construcción de un nuevo modelo deportivo vasco habla

su eficiencia las estructuras competiciones adaptando los formatos a la realidad socioeconómica actual las necesidades las expectativas de los agentes

traducirlas esas hay que llevarlas a documentos estratégicos de actuación y es lo que ni más ni menos estamos tratando de hacer

hemos presentado para su aprobación en este pleno es decir es dar un panorama claro al deporte que hay que coordinar hay que perfeccionar hay menos recursos o sea tiene que haber una necesidad

de más ideas y de más planteamientos estratégicos de más colaboraciones etcétera de más afinidades con

deportivos a los que antes me he referido y de seguir trabajando en esa mejora progresiva de un modelo que tenemos y que se debe de seguir perfeccionando y progresando además recientemente el tema de la financiación federativa ha estado sobre la mesa se ha tratado

en un interesante curso sobre nuevas fuentes de financiación las federaciones deportivas ha habido importantes aportaciones y conclusiones que entendemos que el gobierno podrá recoger

en relación con temas como las licencias en relación con el patrocinio en relación con el mecenazgo bien

el gobierno vasco el que debe ayudar a ello y es el que lo debe de enfocar

en la comisión de diciembre pero esperamos ahora

catorce sea un año de realización de ese documento de ese informe por parte del gobierno

y de su debate o de su análisis para las propuestas o para las

hemos visto bien claro que la enmienda de transacción en eso se centra

la consejera les respondía a la interpelación que

decía casi lo mismo en relación con su compromiso

eso que era un compromiso o una serie de valoraciones o de disposiciones pues hay que explicarlo

a cabo y traducirla en un documento estratégico que bien puede ser aprobado después del verano y que podamos debatir a finales de año en este parlamento muchas gracias

explicar que estábamos básicamente de acuerdo con la moción planteada por el pp que este es un asunto ya debatido en comisión que en aquella comisión hubo un empate puesto que se plantearon dos transaccionales una transaccional firmada entre el grupo popular y el grupo nacionalistas vacos y otra transaccional firmada entre el grupo socialista

pues hubo un empate que el señor barrio con la presentación de esta interpelación y de esta moción quería romper nosotros vistas las enmiendas transaccionales de los grupos

de ambas transaccionales para lograr romper ese empate cosa que finalmente parece ser que hemos logrado

creo que ha sido únicamente el señor barrio quien se ha acercado a upyd para poder firmar esa transaccional

con lo cual únicamente puedo decir que el señor barrio ha explicado perfectamente el contenido de esa transaccional coincido en un punto con eh bildu

damos la enhorabuena al señor barrio y no solo al señor barrio sino a upyd que

gracias a esta transaccional que nosotros presentamos en su momento hemos conseguido romper ese

y enhorabuena a upyd y a todos los grupos inteligentes que vayan a votar a favor de esta iniciativa perfectamente razonable

gracias presidenta y buenas tardes a todos señores parlamentarios señor lehendakari

que lo hicimos en diciembre por lo tanto si por una vez mantenemos la coherencia vamos a decir todos lo mismo que dijimos en aquella comisión

estamos todos de acuerdo con que hay que aportar y ayudar de una forma económica al deporte en este caso al deporte vasco para que pueda continuar y por lo tanto el grupo socialista ha firmado la enmienda transaccional en este caso que la señora ubera de eh bildu que es el mismo grupo con quien lo firmamos en aquella comisión es verdad como dice el señor maneiro que aquel día decayó todo porque faltaba el señor maneiro

porque claro gracias a él aquel día decayó y gracias a él hoy sale adelante por lo tanto esa es la explicación

no queriéndole quitar importancia porque es verdad que el deporte vasco necesita ayuda económica porque es verdad que han bajado las partidas presupuestarias y ha empezado a recibir menos dinero producto de muchas cosas y probablemente también de la situación económica que nos encontramos pues

aquel día en la comisión pero es verdad como ha dicho la señora ubera que al final no se sabe muy bien si aquí venimos a defender el deporte o qué venimos a defender porque las dos enmiendas

que le doy las gracias al señor barrio porque encima ha añadido una de las cosas que yo planteaba

es verdad que planteamos todos los mismo todos planteamos la preocupación por el deporte vasco todos planteamos la necesidad de aumentar la financiación y todos entendemos que la pública

en colaboración con las administraciones implicadas con las entidades deportivas con los clubes

pero también es difícil cuando se intenta llegar a un acuerdo poner por encima

porque yo desde luego hubiera podido firmar su enmienda señor barrio porque no estoy en contra del contenido de la propia enmienda

apoyará pero tiene que entender que yo aquel día en aquella comisión

me parece que el éxito de la financiación del deporte vasco hoy si verdaderamente nos importara el contenido de la iniciativa debiera ser que este hubiera salido por unanimidad ya que aquel día porque faltaba el señor maneiro o porque no hubo acuerdo no sé muy bien por qué pues

porque al final en estos juegos de mayorías de que si está uno

pues como entremos en el juego de intentar rescatar las iniciativas para que acabe saliendo lo que yo quiero porque en el pleno sí está upyd

porque es verdad que esta iniciativa podía haber salido en el momento inicial por tanto el grupo socialista no va a hacer una intervención de desarrollo del aporte del apoyo al deporte vasco porque lo hicimos en su momento en la comisión

en otros momentos pero sí que quisiera que entre todos pudiéramos hacer un ejercicio de política e intentar

más allá de quien firma o no una iniciativa porque esto empieza ya a repetirse y desde luego el grupo socialista no quiere estar siempre en medio de quien apoya o no apoya porque desde luego lo que sí

le voy a dar la razón que esta enmienda o esta iniciativa es repetida

es cierto que durante un tiempo ha existido una especie de consentimiento generalizado de la sociedad en relación a la financiación del deporte por parte de las instituciones públicas

es clara la obtención de recursos económicos para el deporte debe realizarse a través de una financiación desde el sector

así pues la legislación vigente desde mil novecientos noventa y ocho establece claramente cuál debe ser el modelo de financiación de la actividad deportiva y cuál es su fuente

beraz argi dago eredu bat badugula precisamente por ello una de las primeras medidas adoptadas por este ejecutivo en el ámbito deportivo

señora presidenta y brevísimamente en primer lugar para decir para agradecer al señor maneiro la firma conjunta

sensibilidad no ha hecho enmienda y apoya la que hemos suscrito finalmente nosotros

se lo agradezco por seguir hablando del deporte y su financiación

muy importante y lógicamente quedó colgando quedó pendiente entendimos que era necesario una explicación del gobierno

y hemos seguido por esa línea o sea que yo sí que es cierto que usted ha hecho una valoración sobre coordinación y colaboración bueno yo creo que

y de poner en juego a todas sus estructuras desde las institucionales hasta las federativas o las propiamente deportivas estrictamente asociativas e incluso las privadas asociativas pues yo creo

estoy muy de acuerdo y además con preocupación porque ya lo hemos manifestado también en nuestras enmiendas a los presupuestos con el asunto de los presupuestos esqueléticos ahí tiene usted razón por eso mismo he hablado antes vamos a ver si somos capaces de tener ideas

ideas materiales pero también ideas estratégicas ideas de colaboración hemos hablado de lo que la escuela vasca del deporte realizaba en sus conclusiones en sus análisis hablando de todo hablando de la financiación pública pero hablando

de las licencias etcétera hay que estimular esas ideas esas sinergias entre todo ese colectivo deportivo vasco tan amplio tan importante tan ejemplar

que de todo ello debemos hablar estamos estimulando ese diálogo en este caso a través de una actuación previa del gobierno que es el que tiene que responder en primer lugar en relación con estas cuestiones estamos hablando de no continuar como estamos estamos hablando de mejorar y de avanzar

yo creo que ya tenemos un acuerdo para empezar a que el gobierno

ese trabajo y de alguna manera yo creo que también usted se involucrará de ese debate después que tengamos en relación

yo sencillamente a la señora rojo le entiendo efectivamente agradezco

que usted nos ha manifestado y me manifestó en comisión y también lo ha hecho a través

yo lo he recogido en sentido constructivo

hacía una reflexión sobre repetir los debates no es repetir este debate este es continuarlo porque quedó inconcluso quedó abierto en la comisión

el texto instando al gobierno a trabajar al fin y al cabo

lo que quedó sin acabar en la comisión del dieciséis de diciembre muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

esaten dena políticas públicasentzako beraz

las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva

de la guerra civil y de la represión de la dictadura entre estas medidas podrá incluirse

sí gracias presidenta buenas tardes

nos plantea que se aplique en euskadi una ley española en concreto reivindica la ley española de

y concretamente el artículo quince de la misma que dice lo que dice es decir

reivindica una ley español aprobada en el año dos mil siete que se aplique también en euskadi nosotros estamos de acuerdo con la ley de memoria histórica y queremos que se aplique en euskadi efectivamente porque compartimos

y en concreto también el artículo quince de la misma que dice lo que dice en relación a los símbolos y monumentos públicos punto uno las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación

de la guerra civil y de la represión de la dictadura entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas o el punto número dos que lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones

protegidas por la ley en fin o el punto tres y el punto cuatro compartimos por lo tanto el contenido de esa ley y queremos que se aplique en euskadi de acuerdo por lo tanto

en este mismo parlamento en el año dos mil once donde por cierto hubo unanimidad de todos los grupos en relación cuestión esto es lo que hice en nuestra enmienda básicamente queremos que el parlamento

tomando las medidas oportunas para la retirada en el ámbito de sus competencias de escudos insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación

en los edificios y construcciones de carácter público así como a facilitar medidas para la retirada en los edificios y construcciones de carácter privado por lo tanto el objetivo nuestro y lo que pensamos que debe hacerse es impedir que haya ningún tipo

de la sublevación militar franquista de la guerra civil o de la dictadura este es el objetivo de upyd impedir que haya ningún tipo

obviamente quién es el grupo qué es el grupo qué significación tiene el grupo que plantea precisamente esta iniciativa quién nos plantea

quién nos plantea que no se exalte o que se impida la exaltación de la dictadura y del régimen franquista pues el grupo que nos plantea esta iniciativa son los que más se parecen a los dictadores que

los más parecidos a los dictadores de franco

y efectivamente eh bildu tiene la desfachatez de hablar de memoria de hablar de verdad de hablar de justicia

y la poca vergüenza de hablar de crímenes y de reivindicar la convivencia de hablar de derechos humanos

de rebelión militar de cruel violencia

e incluso pone por escrito aquello de afrenta para numerosas víctimas precisamente los defensores del tiro en la nuca estos son los que nos dicen a nosotros impulsar todas las medidas necesarias para impedir que haya ningún tipo de exaltación del régimen franquista y de la dictadura esto es un ejercicio político absolutamente insoportable hablan de alzamiento militar ante un gobierno legítimo los mismos que no condenan a eta los mismos que han defendido a eta esa banda terrorista que hace apenas cinco años amenazó de muerte al gobierno legítimo de patxi lópez

inaceptable e insoportable que tenemos que escuchar los representantes democráticos es decir los grupos y los parlamentarios que no pertenecen

que hablen de víctimas que hablen de memoria que hablen de justicia los mismos que se niegan a condenar a eta esta es la desfachatez y esta es la poca vergüenza

la representante de eh bildu hable de lectura crítica y que condene y critique

franquista esto es lo que a nosotros nos parece inaceptable seguramente algún otro portavoz le dirá cosa parecida en fin que hablen ustedes de docenas de asesinatos por motivos ideológicos los mismos que se niegan a pedir

esa banda terrorista que ha provocado centenares de asesinatos en euskadi de personas que pensaban distinto a lo que pensaban y siguen pensando los representantes políticos de la banda terrorista eta esta es la vergüenza

del que ustedes vuelven a hacer gala eh bildu presentado una iniciativa impedir que haya ningún tipo de exaltación del régimen franquista precisamente los que más se parecen al régimen franquista los que han defendido la dictadura

político efectivamente eh bildu propone que se impida la exaltación

exaltando la dictadurade eta esa es su coherencia esa es su desfachatez por cierto a diferencia de todos los demás

todos los parlamentarios democráticos presentes en esta cámara condenan la dictadura de franco y condenan la dictadura de eta

y todos condenamos la dictadura de eta excepto ustedes que son los únicos que no condenan la dictadura

arratsalde on guztioi este es un país no solo de memoria sino de memorias y creo que el que me ha precedido en el uso de la palabra así lo ha puesto claramente de manifiesto yo también había tomado nota a medida que usted desarrollaba su discurso y algunas contradicciones tremendas

de la política porque si la dictadura franquista dejó un amplio campo simbólico en nuestras calles tratando de borrar el régimen democrático y constitucional de la república pero también tratando de borrar el nombre de todas aquellas personas que habían representado la república en instituciones en sindicatos multitud de asociaciones y de todas aquellas personas que murieron en la guerra civil y posteriormente en la cárcel en el exilio

y estamos de acuerdo desde el grupo socialista en que hay que cumplir con la ley de memoria faltaría más nadie nos puede dar a nosotros lecciones en esta cuestión lo demostramos desde el gobierno de españa y lo demostramos desde el gobierno vasco porque la gestión que hicimos cuando estábamos en el gobierno fue ampliar la política de memoria histórica

cuando llegamos nos encontramos que solo había un convenio con aranzadi para buscar fosas

en la guerra civil y continuamos por supuesto con esa política de búsqueda de las personas pero desde luego ampliamos y creamos el mapa de fosas

el catálogo de vestigios acompañados por el parlamento hicimos

para que hiciera un estudio científico sobre los años de la represión franquista por lo tanto

de ese catálogo que hizo el gobierno de ese dictamen que salió de la comisión mixta entre eudel y gobierno

unas recomendaciones de cómo se puede acometer desde los municipios

pero yo sí le pediría al grupo de eh bildu la misma firmeza que usted ha hecho gala hoy aquí de retirada de estos vestigios del franquismo la misma con otros debates que se dan en esta cámara con respecto a las víctimas del terrorismo y la misma firmeza con una revisión crítica del pasado que usted exige para el franquismo

exigencia se puede hacer con otros períodos históricos mucho más cercanos porque parece que ustedes tienen menos reparo en hablar del pasado más lejano en el tiempo aunque muy cercano en muchas personas que han sufrido la represión y en la guerra civil pero desde luego

no quieren ni hablar de algo que ha sido antes de ayer por lo tanto nosotros compartimos la iniciativa cómo no porque compartimos la gestión y la gestación que da origen a esta iniciativa pero creemos que hay que exigirles también la misma contundencia

que hoy ha hecho usted gala con otras cuestiones vinculadas a eta a las víctimas del terrorismo y al sufrimiento de este pueblo causado

yo cuando era crío pasaba en los años cincuenta cuatro veces al día para ir al colegio por la plaza elíptica bilbaína y en aquellas épocas años cincuenta

en la parte más alta del edificio de la hacienda española el escudo fascista de la españa franquista con su lema de españa grande y libre una grande libre

hoy después de cincuenta y cinco años todavía el escudo sigue en el mismo sitio vigilando el pasear de bilbaínos y bilbaínas

que o nos hemos confundido o que no hemos aplicado la ley de la memoria con el excesivo celo que teníamos que aplicar o que alguna ley se nos ha escapado en el camino

es porque hace cuarenta años el dilema era la reforma o la ruptura esta sociedad eligió la reforma y evidentemente

a las escenas típicas de revolución en las que se ve cómo se arrastran

de lenin o de stalin o se ve ese icono del tiempo de cuando tiran la estatua de sadam hussein en irak que marca en el tiempo un poco la caída de la dictadura aquí se eligió para bien o para mal el tiempo y la historia lo dirán

fue mucho más lenta y la reforma conllevo en que hubo una época de adaptación y en que hubo una época de convivencia entre los últimos estertores del franquismo y los primeros

tirar todos los símbolos porque luego también vimos unas fotos que así como todos

por dentro vaciadas y se podían arrastrar como se veía en las fotos entre dos personas por la calle pues el dictador franco se las hacía de hormigón con un caballo debajo y no me imagino a

derribar una estatua en una calle pública porque todavía no estaba el horno para bollos yo creo que eso puede disculpar la lentitud aunque no tiene ningún tipo de disculpa el hecho de que ochenta años casi después del comienzo de la guerra civil cuarenta años casi después de la muerte del dictador

bastantes placas bastantes insignias bastantes monumentos

a retirarlas por tres razones en primer lugar porque esos símbolos eran

y evidentemente una sociedad libre no se pueden seguir manteniendo

artículo se ha leído la ley del dos mil siete de memoria histórica que obliga o que recomienda también a que se quite cualquier tipo vestigio en lugar público

histórico sentimental es pensando en aquellas gentes que defendieron

la legalidad del primer gobierno vasco de josé antonio aguirre lecube y en el fondo que hicieron frente al fascismo no hay que olvidarse

fue el primer lugar de europa donde se intentó frenar el fascismo no me imagino yo a un viejo gudari paseando por las calles vascas

tampoco me imagino una visita que suele ser frecuentes de los hijos o los nietos

ochenta años después de la guerra todavía hay símbolos del ejercito que

todavía se mantienen los elementos fascistas lo tenemos todo en el informe del gobierno vasco del dos mil doce

la dirección de derechos humanos junto con eudel lo ha pasado a todos los ayuntamientos simplemente se trata de aplicar estos está tan detallado que incluso habla del coste que también puede llegar a ser un problema habla incluso

del instituto nacional de vivienda son cuatro euros una placa un rotulo de una calle

política o administrativa de seguir hacía adelante con ella yo pensaba que íbamos a coincidir todos que iba a ser una votación de estas

pero no sé qué va a votar el partido popular pero para ello les voy a recordar que hace cuatro días bueno voy a decir que hay dos formas de cumplir con esta ley una por voluntad que es la que tenemos nosotros y otra por acatamiento legal que es la que puedan tener aquellos nostálgicos y no va por ellos evidentemente

hace cuatro días el ayuntamiento de burgos iba a dejar el convento de san juan para una exposición que se titulaba un hombre y el resurgir de burgos yagüe yagüe era un general fascista conocido como el carnicero de badajoz porque en badajoz fusiló

porque también de fiscal militar en málaga también se llevó por delante a varios miles de malagueños republicanos volviendo a burgos pues en burgos el ayuntamiento iba a ceder el convento de san juan para hacer oposición pero antes de cederlo tuvo la prudencia el ayuntamiento del pp de burgos evidentemente

y el servicio le dijo que la cesión de espacio público para la exposición

por la que se reconocen los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia

una firme voluntad de eliminación de todos los símbolos fascistas hay que aplicar

muchas gracias señora presidenta buenas tardes de nuevo

mantenido sobrepasado y sobrepasado es decir en esta cámara votamos a favor del cumplimiento de la ley de memoria histórica como ha recordado el señor maneiro por unanimidad y usted aprovecha el momento pero en fin

la primera que sea bildu quien dice que hay que suprimir no sé qué

mientras ellos mantienen la llama viva el retrato en todos sus tamaños y manifestaciones

la escolta moral y política el encumbramiento la exaltación de un cúmulo de asesinos que formaron y forman parte de una organización terrorista

y en la democracia es cuanto menos un sarcasmo muchos caudillos son venerados

verles a muchos de ustedes detrás o delante de retratos

de extorsionadores de secuestradores es algo

es un hecho que constatamos habitualmente es decir que usted venga aquí indignada por no sé qué deficiencias

de la aplicación de la ley de memoria histórica no tiene sentido si usted misma no efectúa una introspección una evaluación

análisis de comportamientos en el sentido de los que usted reclama esta es una cuestión debatida aprobada y es una cuestión vieja hace tres años se aprobó una proposición no de ley por unanimidad de esta cámara proponiendo

la ley cincuenta y dos barra dos mil siete que ya todos hemos mencionado se encargó la elaboración de un catálogo se constituyó una comisión técnica para la retirada de los símbolos franquistas y como dice el propio dictamen

en euskadi aquella presencia pública de símbolos franquistas lo dice el gobierno vasco fue de forma considerable corregida

de mil novecientos setenta y nueve recientemente con motivo de la puesta en marcha de la labor oficial para el cumplimiento del artículo quince símbolos y monumentos públicos de la ley

la dirección de derechos humanos del gobierno vasco encargó la elaboración de un catálogo de símbolos y monumentos públicos existentes en euskadi que supongan una exaltación de la guerra civil y de la dictadura bueno todo lo que

ese catálogo el objeto de la comisión es el análisis del catálogo y la realización de recomendaciones sistematizadas dirigidas a las instituciones públicas de cara

franquista en euskadi dice que la clasificación de símbolos aún presentes recomendaciones generales

a ayuntamientos a los gobiernos a las diputaciones a los juzgados dada la imposibilidad de tratar como

que actuar de esa forma se facilitan unas recomendaciones orientativas en todas esas categorías incluyendo

son cuestiones que están ahí son cuestión que se van cumpliendo sobre las que se están actuando desde las diferentes instituciones que progresivamente se van cumpliendo los postulados de la ley van desapareciendo la inmensa mayoría de la simbología franquista o de la dictadura o del alzamiento

como también dice la propia ley han existido o existen razones arquitectónicas

artístico religiosas además que son razones protegidas por la ley

también la ley siempre que sean de estricto recuerdo personal o privado

cuestiones que se aplican y que son de ley lo recordaba

los datos de la administración general del estado sobre los más de seiscientos ocho

retirados más del ochenta y cinco por ciento de lo que se ha retirado en cumplimiento de la ley

decía él es porque existen procedimientos muy largos costosísimos o de mucho impacto pero que también la voluntad muchos de ellos ya están en marcha a la espera de obras de

o sea yo creo que la enmienda de transacción está ahí ha puesto las cosas un poco más en su sitio

la sensibilidad que tenía la enmienda del pnv del pse o

puesto las cosas más en su sitio hablábamos del catálogo

el catálogo que encargó en dos mil once el parlamento vasco es un punto de referencia

existen determinadas apreciaciones o elementos que tienen un carácter absolutamente discutible y distorsionador

muy discutible muchos subjetivismos bueno hay cuestiones

descriptivas que enmarcan símbolos o monumentos que ahí están ya que ahí han estado fundamentalmente pero

como un elemento de referencia o de seguimiento o de análisis podría servir debemos de hablar de que determinadas obras o símbolos necesitan simples correcciones o modificaciones el borrado de alguna fecha el borrado de alguna inscripción está bien claro que todo eso ya

y las que quedan por hacer se harán en cumplimiento de la ley a la que hemos aludido

de la plaza de españa de la actual plaza de españa de vitoria tiene que ver con la guerra civil

o que es necesario quitar el nombre de ramiro de maeztu intelectual de la generación del noventa y ocho de una calle de vitoria pues como ustedes comprenderán creo que está distorsionado o mal concebido ese catálogo o que el portal de legutiano

que tiene que ver con la guerra civil legutiano es una preciosa localidad y municipio alavés que se merece el nombre de una calle desde luego

porque haya habido una batalla en su momento en las cercanías legutiano es legutiano y puede tener perfectamente una calle como la que tiene en vitoria el planteamiento del catálogo

sin sacar las cosas de quicio es lo que hay que hacer las cuestiones hay que cumplir la ley y eso es lo que de nosotros vamos a apoyar hemos apoyado y apoyaremos siempre y como estos ejemplos hay algunos absolutamente discutibles cargados de subjetividades

la enmienda de transacción pide al gobierno vasco que complete la retirada de símbolos franquista donde los haya tomando como referencia entendemos que las discutibles o las subjetivistas

no son referencias pero muchas de las cosas sí y que

proponga medidas para facilitar la retirada de los símbolos cuando estén

esto subsana además la rotundidad y la injusticia que podía suponer

propiedades privadas es decir en muchos casos es muy complicado casi imposible

fachadas enteras o demoler inscripciones en algunos sitios inaccesible iglesias algunas entre ellas pues imagínense ustedes que

arquitectónica estructural lleve a retirar las ayudas a instituciones públicas eso puede llevar a que cáritas cáritas ejemplo de institución de solidaridad y de ayuda

esa sí que sería la mayor medida antisocial

por una imposibilidad arquitectónica de esas características bueno

la portavoz de eh bildu hablando de dejadez y hablando de responsabilidad política ahora en relación

dejadez y de responsabilidad política hablando de exaltaciones pero

su particular ley de memoria histórica usted no ha aprobado todavía en su organización el artículo quince en relación con los símbolos

nos compara con el régimen franquista y la falange actual que por cierto mantiene

pide el voto para upyd no lo pide para euskal herria bildu

maneiro yo a veces pienso que no se escucha lo que décimos he estado un buen rato hablando de memorias en plural y hablando de relatos en plural y se nos dice que no queremos hablar literalmente se nos dice eso que no queremos hablar no voy a hacer una intervención dura contra el partido socialista porque confío en que vamos a trabajar conjuntamente

puntos de encuentro pero realmente resulta un sarcasmo que se nos diga que no queremos hablar cuando seguimos manteniendo vacía una silla en una mesa para hablar yo no sé si lo que se nos pide es que hablemos como voceros de mercadillo o lo que se pretende es hacer un debate serio

o si lo que se quiere es hablar de verdad porque lo que queremos es hablar de verdad

y estamos dieciocho meses en este parlamento oyendo un lenguaje de guerra

estamos llamando al encuentro al diálogo

foro que tengamos a nuestra disposición aquí y fuera de aquí dentro y fuera en las ponencias de paz y convivencia en los foros sociales

memorias realmente quieren oír

o le es suficiente con la memoria que ya tienen grabada que ya tienen fosilizada en sus cabezas donde solo hay un relato único y monolítico si realmente vamos a hablar de memorias sentémonos y no hagamos como un vocero de mercadillo

quién da el insulto mayor quién pone la picota de una manera más contundente

y eso es lo que hay y no creo que nos hayan oído hablar de conflicto ni de

continuar con un episodio que es realmente duro que es difícil y que ha afectado absolutamente a todo este pueblo como afectó como afectó la dictadura franquista que todo el país somos víctimas de esa dictadura se cerraron escuelas se purgaron maestros se hizo un genocidio lingüístico se quitaron a trabajadores de sus puestos de trabajo

estamos hablando de eso hoy estamos hablando de eso tengan el coraje de hablar de eso y de escuchar eso

hoy y mañana también y la otra y todas y todas

que no queramos hacer una memoria completa lo estamos reclamando día tras día hacer una memoria completa

no vamos a tapar la mitad de la fotografía eso es lo que no vamos a hacer

porque parte de la fotografía se quiere tapar la presente y la pasada

tenga problemas y espero que no señor barrio tenga problemas para decir

que ha afectado tanto tenemos que darle carpetazo de una vez para siempre y yo confío en que hoy también tengamos unanimidad incluso aquellos partidos

a ustedes a ustedes a los dictadores a los dictadores vascos es decir ustedes que replica

nosotros hemos escuchado perfectamente lo que usted ha dicho y por eso los partidos políticos democráticos les hemos recordado que son ustedes los a día de hoy que no condenan la dictadura de eta no han escuchado ustedes bien no han escuchado ustedes bien que todos criticamos y condenamos

y ustedes sin embargo no condenan la dictadura de eta no se dan cuenta ustedes de esto no sé les cae la cara de vergüenza estamos todos de acuerdo con la aplicación

estamos todos de acuerdo queremos que se impida que haya ningún tipo de exaltación del alzamiento militar de la dictadura franquista de la represión franquista de la guerra

exaltar hechos tan repugnantes como aquellos estamos todos los partidos políticos democráticos de acuerdo con eso cuál es la excepción que ustedes no condenan los asesinatos de eta ustedes no condenan a

este debate no tiene ningún misterio se lo he dicho antes es un sarcasmo es un cinismo

que ustedes hablen de memoria de justicia de reparación

que lo que han conseguido es ponerse en evidencia hacer el ridículo más espantoso dejar bien claro a la sociedad que son ustedes vestigio del franquismo son ustedes porque los demás somos demócratas se lo han dicho otros grupos es un sarcasmo absolutamente

los defensores de los dictadores de eta los defensores y exaltadores de los dictadores de eta los justificadores de niños mujeres y hombres esto es lo que hay señora mintegi esto es lo que hay

que ustedes no condenan esto sí que es lo que hay esto sí que es lo que hay

traigan aquí este debate que intenten darnos lecciones al resto de democracia y de convivencia precisamente los que no creen en la democracia precisamente aquellos que han acompañado durante décadas a una banda terrorista este es el sarcasmo esta es la vergüenza

pero es que es muy evidente se ha puesto de manifiesto que es lo que ocurre en este parlamento nadie va a votar en contra de esta iniciativa nadie va a abstenerse ante esta iniciativa todos vamos a votar a favor porque todos criticamos y condenamos la dictadura

otra vez en evidencia que son ustedes los únicos que no condenan la dictadura de eta qué más quisieran ustedes que hubiera aquí un partido político

a franco qué más quisieran ustedes pero no lo hay estos son los hechos esto es lo que hay señora esta es la realidad ustedes por lo tanto han hecho otra vez el más espantoso de los ridículos y se han puesto en evidencia
el resto de parlamentarios democráticos presentes en esta cámara eskerrik asko maneiro jauna mendia andrea zurea da hitza

y queremos que no quede ni un solo vestigio de ninguna de ellas y nos gustaría escucharlo de su boca de la de su grupo en algún momento en este parlamento

el franquismo y sus crímenes y sus símbolos que todavía perduran en las calles de euskadi yo como somos el único partido que no ha arremetido contra bildu quiero explicar el por qué

entonces entiendo que políticamente pues se pueda coger el toro por los cuernos darle la vuelta y volver al tema de eta pero yo que también estamos de acuerdo evidentemente que estos señores tienen que condenar

se le da la vuelta al argumento pues me parece que es posible pero nosotros si no hemos dicho nada de eso es porque nos hemos atenido

lo que hay que hacer aunque también entiendo que por política se pueda dar la vuelta y se pueda otra vez volver hablando

no tenía nada que ver con eta era históricamente un tema separado en el tiempo era un tema separado y creo que no beneficia a nadie la mezcla porque las comparaciones generalmente suelen ser odiosas

ramírez escudero de abogado defensor

no se ha defendido porque no ha podido defenderse

y usted ha salido un poco a decir cuales son o no los debates del franquismo hemos hablado en este parlamento cientos de veces

y de este tema por unanimidad hace tres años o sea que en ese sentido

hemos valorado la enmienda transaccional que vamos a votar efectivamente pues el catálogo hemos visto que tiene muchos puntos débiles muchas ineficiencias o subjetividades

con muchas de las cosas que sí que plantean y que identifican pues esos símbolos y esos vestigios

y que se sigan facilitando las medidas para facilitar la retirada de los mismos

propietarios privados que no pueden que necesitan ayuda que se les ayude

con normalidad de la ley de memoria histórica si la aprobamos hace tres años pues la seguimos aprobando ahora pero señora

como decía yo antes usted no se ha defendido antes porque no puede defenderse no puede defenderse

no ha hecho su propia ley de memoria histórica usted sigue con los vestigios usted sabe además que la ley de memoria histórica se va cumpliendo se va cumpliendo progresivamente en la medida que los ayuntamientos que las diputaciones que los juzgados que las instituciones que tienen algún símbolo lo pueden ir haciendo

que la ley de memoria histórica se va cumpliendo pero a usted le fastidia que eso ocurra ustedes la verdad es que siguen echando de menos

y eso forma parte de sus contradicciones forma parte de sus contradicciones y esas contradicciones solamente ustedes las tendrán que superar mire esto es memoria histórica reciente garitano

señor garitano que es el diputado general de gipuzkoa

retrato de un criminal delante suyo y detrás suyo por si fuera poco apoyando a un criminal

esto es el incumplimiento más flagrante de todas las memorias históricas éticas democráticas incluso humanitarias

y un insulto y aquí no hablamos de una estatua o no hablamos de un escudo o de un cuadro aquí hablamos de un diligente político y la exaltación de un símbolo absolutamente y absolutamente antidemocrático esto es lo que ustedes tienen que quitar del medio de una vez esta es la reflexión que ustedes tienen que hacer de una vez muchas gracias

buenas tardes señorías mi grupo parlamentario los socialistas vascos traemos hoy a este pleno una proposición no de ley para prevenir y evitar la discriminación y el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género

con el grupo nacionalista vasco y con el grupo eh bildu que considero va a permitir seguir avanzando en lo referente a la no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en nuestros centros educativos

ante la comisión de igualdad del congreso de los diputados y fue apoyada por unanimidad por todos los grupos de la cámara absolutamente por todos todos los partidos consideraron importante apoyar esta iniciativa por considerarla necesaria para seguir avanzando en impulsar una educación en la convivencia y en el respeto a la diversidad y a los derechos de todos los ciudadanos

si tenemos en cuenta que nos encontramos en la actualidad en un contexto de hostigamiento y persecución de esta población tanto en el ámbito europeo como mundial

el de rusia y uganda mi grupo parlamentario adecuado presentar esta iniciativa ante el parlamento vasco con el fin de avanzar también en nuestra comunidad autónoma en el ámbito de la prevención del acoso escolar en los jóvenes lgtb tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario

que el cuatro de febrero de este año en el parlamento europeo se aprobó por holgada mayoría por trescientos noventa y cuatro votos a favor

un informe el informe lunacek que reclama acciones para defender a un colectivo

haberse sentido discriminado y un cuarto reconoce haber recibido amenazas o ataques físicos y así ha aprobado elaborar un plan para proteger los derechos fundamentales de gays

al considerar necesario asegurarse que en europa no se tolera la homofobia toda una propuesta de hoja de ruta contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género el partido popular en la cámara de estrasburgo votó dividido votando en contra

y solo sesenta y nueve parlamentarios populares respaldaron un documento que previamente se había aligerado para no despertar las susceptibilidades de los más conservadores

reclama entre otras medidas que los gobiernos reformen

sobre crímenes de odio contra el racismo y la xenofobia para incluir los ataques por razones de discriminación sexual anima a la comisión europea a asegurarse de que los derechos de movimiento de las familias incluyan

de juventud y educación a promover la igualdad y la no discriminación por motivos de orientación sexual identidad de género en todos sus programas específicos en los colegios

y no se trata de una directiva de obligado cumplimiento su aprobación supone

y una derrota importante para los grupos ultra conservadores que en las semanas previas a su aprobación

por el gobierno vasco se presentó para finales del pasado año el plan director para la coeducación y la prevención de violencia de género en el sistema educativo

que dentro del mismo desde el texto del borrador hasta el texto del plan presentado finalmente se incluyeron modificaciones que recogen puntos incluidos

por mi grupo parlamentario y yo me alegro que se hayan tenido en cuenta y hayan sido incluidos como los referentes a ampliar los sistemas de recogida

incluyendo todo tipo de agresiones sexistas sexuales homofóbicas lesfóbicas y transfóbicas establecer un programa de prevención

incluir el contenido de la formación del profesorado tanto inicial como permanente la formación específica en materia de atención educativa a la diversidad y contra el acoso escolar

y también en el ámbito de la consejería de educación que se otorgue el currículo de todas las etapas educativas una atención especial al derecho a la igualdad de trato y no

en que proceda de enseñanzas en materia de igualdad de trato y no discriminación por eso y teniendo en cuenta que corrigiendo el texto del borrador se incluyeron

en nuestra iniciativa hemos firmado una transaccional para seguir desarrollando el mismo y avanzar en la implementación en el ámbito educativo de dicho plan a la mayor brevedad posible pero era necesario completarlo también con la detección de dichos casos desde el ámbito sanitario

que no trataba el plan de coeducación antes indicado

por eso se ha incluido un punto en la transaccional donde el parlamento vasco insta al departamento de salud y consumo a que desarrolle acciones para atender tantas consecuencias tenga para la salud el acoso escolar

que podrán consistir en el desarrollo de planes y programas de adecuación sanitaria ello es necesario

en los centros educativos no son espacios seguros para los jóvenes homosexuales bisexuales y transexuales y eso es un problema de una magnitud muy dolorosa

en lo referente a la igualdad de trato y a la igualdad de oportunidades de las y los jóvenes

vuelve a meter la religión por expreso deseo de la conferencia episcopal y elimina del currículum escolar el respeto a la diversidad sexual y familiar que aparecía en la educación para la ciudadanía lo que evidentemente puede suponer

y propiciar la discriminación y acoso escolar por orientación e identidad sexual señorías el suicidio es una de las principales causas externas de fallecimiento en los adolescentes y jóvenes según los datos publicados por el instituto nacional de estadística

han sufrido violencia en su centro de estudios incluso el veinte por ciento lo han sufrido en el seno de su propia familia un informe publicado por la federación estatal el lgtb y el colectivo

ha puesto de manifiesto la problemática existente entorno al acoso escolar homofóbico y el riesgo de suicidio que ello conlleva en adolescentes y jóvenes lesbianas

según dicho informe el acoso escolar homofóbico lleva

dicho acoso a plantearse el suicidio de ellos el diecisiete por ciento lo intentó el veintiséis por ciento ha sufrido agresiones o amenazas

y el cuarenta y dos por ciento no recibió ayuda de ningún tipo en un centro educativo sin embargo el estudio efectuado por la federación estatal el lgtb y el colectivo cogam sobre esta realidad

en otros países occidentales fundamentalmente en francia dado que nuestro país no era posible conocer dentro de los suicidios de adolescentes cuántos pudieran ser derivados

de acoso escolar a personas lgtb al no existir datos fiables

consideramos también que la orientación sexual y la identidad de género

no lo percibe como tal por lo que es fundamental actuar y modificar el entorno ya que nadie es infeliz o incluso se suicida por ser lesbiana homosexual bisexual o transexual sino por sufrir el acoso de la discriminación día a día es necesario seguir sentando las bases de un sistema educativo en el ejercicio pacífico de derechos

de la ciudadanía con el fin de hacer efectivos los propios derechos y permitir que los demás ejerzan los suyos en una sociedad cada vez más diversa

esa es la realidad que tenemos es la realidad que viven muchos jóvenes y sus familias lgtb en centros escolares también en nuestra comunidad autónoma

con la finalidad de contribuir a proporcionar unas políticas no solo educativas

dirigido contra las y los lgtb jóvenes es de vital importancia atajar esta realidad a tiempo trabajando en la detección y apostando por la prevención por ello mi grupo parlamentario ha firmado la enmienda transaccional

y el grupo eh bildu y por tanto vamos a votar a favor de la misma y animo a los demás grupos a votar favorablemente por ella nada más y muchas gracias

estamos hablando de una estructura de poder por la que la heteronormatividad penaliza cualquier disidencia real o figurada

gays lesbianas bisexuales transexuales intersexuales

es fundamental trabajar sobre una base la coeducación para poder garantizar un modelo de escuela basada en el desarrollo integral de las personas

que eduque en el rechazo a toda forma de discriminación y violencia machista y que posibilite una orientación académica y profesional no sexista contando con la participación y la implicación

impulsa la educación afectivo sexual superando planteamientos biologicistas trabajando diferentes aspectos

el deseo como una emoción propia y construida e importante para la felicidad personal y relacional la tracción

así como las relaciones afectivas y o sexuales desde el deseo el cuidado del bienestar y lo compartible no desde el acoso el control el abuso el sufrimiento o la violencia machista así está recogido en el plan estratégico de coeducación del departamento de educación política lingüística y cultura que ha presentado recientemente

va a favorecer su desarrollo por considerarlo una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad igualitaria y por tanto antipatriarcal que perseguimos siempre y cuando se cuente para ello con los recursos necesarios para su correcto desarrollo

es por ello por lo que hemos firmado una enmienda de transacción con los grupos nacionalistas vascos y socialistas vascos para desarrollar y ejecutar este plan en su totalidad

las identidades sexuales y las elecciones afectivo sexuales que trasgreden

en el aula lo que hace que en muchos casos se oculten y se vivan con sufrimiento behin baino gehiagotan urkullu lehendakariak gogoeta hauek azpimarratu izan ditu

sexuaren araberako orientazioa baztertzea espero da el plan de coeducación tiene como fin una escuela que promueva modelos de convivencia basados en la diversidad en el respeto a la igualdad de derechos y de oportunidades de mujeres y hombres

una escuela que ayude al alumnado a vivir sus relaciones desde la igualdad y el respeto superando actitudes violentas machistas homófobas

y todo ello con la ayuda y colaboración de todas las personas que conforman la comunidad educativa me gustaría reseñar la alta participación en la elaboración de este plan como profesorado personal asesor de inspección de de la upv ehu del departamento de educación

de emakunde del departamento de empleo y asuntos sociales servicio berdindu diputaciones forales eudel ararteko consejo escolar de euskadi

sindicatos personas investigadoras de la coeducación y de la prevención de la violencia de género así como muchas aportaciones recibidas de otras muchas asociaciones e instituciones

en cuanto a los términos recogidos en la transaccional dinamice el desarrollo y continúe implementando hasta su total ejecución el plan de coeducación decimos dinamice y continúe

actualmente se está trabajando con berdindu en formación del profesorado de educación primaria y secundaria

así como con las personas responsables de coeducación de los centros escolares y de las personas representantes de igualdad en las onr así como presentación de programas en educación secundaria a través de los berritzegunes colaboraciones con las upv o coordinación y colaboración con el departamento de salud y consumo

solicitada por uno de los grupos parlamentarios a fin de dar a conocer todos los extremos relativos con la puesta en marcha

el grupo popular comparte la preocupación puesta de manifiesto por

señora sánchez con la presentación de esta proposición no de ley por la que se reclamaban

la propuesta inicial que la que finalmente ha quedado de la transacción con los grupos nacionalistas era mucho mejor la suya no sé por qué

de ir a una transacción que desnaturaliza el fondo de la cuestión y el objetivo que perseguía su iniciativa pero realmente nosotros compartíamos la necesidad de proclamar medidas de prevención e intervención en el ámbito escolar

de orientación sexual e identidad de género respaldábamos y respaldamos la necesidad de mejorar el sistema de recogida de datos

la detección de casos que permita conocer las causas de suicidio entre adolescentes y jóvenes gays lesbianas transexuales

creíamos que es preciso como usted establecer un programa de prevención específico cuando estamos hablando de acoso escolar por motivos de la orientación sexual entendemos que hace falta un programa de

atendiendo a las circunstancias específicas que viven en las que se desarrollan las personas en las que su adolescencia

se dan cuenta de que su orientación no es la general cuando su orientación sexual la de un chico que ve

considera que eso es algo que debe ocultar

que hoy todavía desde la educación merece un tratamiento específico bien entendemos que

en materia de atención educativa a la diversidad sí se ha dicho aquí pero una formación que mejore la respuesta de los profesores ante casos de acoso pero que garantice también un compromiso activo de los docentes en la prevención de conductas y actitudes

pero eso que al final era el fondo de la cuestión que usted ha traído aquí queda en nuestra medida

pues desneutralizado con la propuesta de transacción que nosotros vamos a votar a favor

nos acusarán de no sé sabe qué la votaremos a favor pero nos parece

un tanto floja más allá de los discursos que aquí suenan muy dramáticos

este plan director para la coeducación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo hombre estaría bueno es decir no aportamos mucho diciendo que se aplique un plan

y que además señora sánchez es un plan para la prevención de la violencia de género y que quiero recordarle que se dice que entre las aportaciones recibidas se destaca

se da por bueno el liderazgo del departamento pero se dice que aquí se implican al personal técnico y político de las estructuras del acuerdo interinstitucional

a las víctimas de violencia doméstica este es un plan que se fundamenta especialmente en la lucha contra la violencia de género efectivamente y para educar en la diversidad y en el respeto de los hombres hacia las mujeres

de violencia doméstica violencia sexual contra las mujeres liderado por emakunde oiga está muy bien y nosotros respaldamos esto pero

que trataba de abordar programas específicos para chicos gays y lesbianas que sufren acoso en la escuela a mí me parece que

la segunda parte de la enmienda de transacción habla de las consecuencias

este tipo de acoso por motivos de orientación sexual y que efectivamente se deberán de prever respuestas específicas hombre qué menos

cuáles son las medidas que este gobierno y que el departamento de educación está dispuesto a poner en marcha más allá de los discursos para atender de una manera específica a lo que son situaciones

en nuestra sociedad y más allá de que ya no le queden prácticamente a bildu letras en el diccionario para hablar

para hablar de un problema muy concreto un problema que tiene que dejarse ya de los discursos

es una condición no es una ideología

tenemos que resolver los problemas de las personas no tratar de utilizar y aprovechar los problemas de las personas para hacer ideología y partidismo me gustaría que aquí algunos cuando bajan a hacer discursos más allá de las letras del diccionario que utilizan para hacer discursos que hasta a mí

me resultan agresivos y que en absoluto comparto creo que deberíamos de verdad

que nos pongan de acuerdo en cuáles son las medidas que una administración tiene la obligación de poner en marcha a través de la escuela para dar respuesta a los problemas que tienen

y creo en mi opinión que la propuesta que ustedes han firmado se queda un poco corta y desde luego muy atrás de lo que
pretendía la propuesta inicial socialista nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

muchas gracias presidenta señor oyarzabal nuestro grupo parlamentario también habría preferido que se hubiera recogido diferenciado en otro plan pero creo que lo que me ha dirigido y me lo ha dicho a mí se lo tendría que haber dicho

yo no he elaborado ese plan evidentemente mi grupo parlamentario no ha elaborado ese plan

meterlo dentro de ese plan fue el grupo parlamentario que está en el gobierno vasco y por tanto creo que ha errado dirigiéndolo hacia mi grupo yo hubiera preferido como usted también ha comentado que hubiera estado recogido en un plan diferenciado pero no ha sido así

de coeducación contra la violencia de género y se incluyó porque

que desde el borrador hasta el texto final que se aprueba

que no se recogían en el momento inicial y que eran puntos que se recogían dentro de la proposición no de ley respecto a este tema y al acoso

por mi grupo lo que no se puede decir que no está es que si se han mentido con posterioridad en un plan aunque no sea

diversificado diferenciado es que no hay nada porque si se ha metido a posteriori hay cosas que están metidas eran puntos recogidos en nuestra

a la hora de aprobar ese plan de coeducación contra la violencia de género de todas formas

y estar vigilantes en la implementación de este plan

a la iniciativa presentada hoy aquí y como lógicamente ese plan de coeducación solamente se refería a lo relativo a la educación

porque también como he indicado en mi primera intervención es importante la prevención no solamente en el ámbito educativo sino también

en el ámbito sanitario para reducir este problema yo sin más agradecer a los grupos que han firmado la enmienda transaccional y nosotros seguiremos desde luego y controlaremos el desarrollo y la

de este plan de coeducación en el futuro para ver si efectivamente desarrolla todo lo relativo a la orientación sexual a la discriminación por orientación sexual hoy en día de género y que genera el acoso escolar

estuvo usted presente el día que se presentó este plan en aquella comisión porque títulos aparte le puede gustar o no allí se dijo claramente que con el plan se impulsa un modelo coeducativo de escuela basado en el desarrollo integral de las personas al margen de los estereotipos y roles en función del sexo que eduque en el rechazo a toda forma de discriminación y de violencia sexista y que posibilite una orientación académica y profesional

educativa tiene esto o no tiene que ver con el tema que estamos tratando y es que encima también en esa misma presentación se dice que es un plan de trabajo que principalmente define objetivos y actuaciones y algunas de ellas están perfectamente definidas ya por tanto pues bueno títulos aparte

yo creo que para compartir esas cosas que usted ha leído no hacía falta un plan eso se daba por hecho efectivamente este plan se puede ocupar de muchas cosas mezclarlas

yo creo que perseguimos no es lo mismoabordar

la violencia de género contra las mujeres que el acoso escolar que sufren gays y lesbianas no es lo mismo y no se puede abordar de la misma manera yo no sé si no he podido explicar suficientemente pero creo que confundir esto es

no saber exactamente por dónde vamos y yo creo que es muy importante que el gobierno además de

en marcha planes para combatir la violencia de género la violencia contra las mujeres sepa que en la escuela hay un problema específico

para aquellos chicos y chicas que no son heterosexuales y que se manifiestan de otra manera

ese problema específico que es al que se refería la señora sánchez cuando presentó esta proposición no de ley es el que en nuestra opinión
queda diluido con esta transacción nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna